no hemos firmado la enmienda todavía pero creo que lo haremos en cualquier caso procedo a hacer

al gobierno del partido popular no le gusta la justicia debe ser porque se le representa como a una mujer con los ojos vendados y porque lleva una balanza en la izquierda porque la espada de la derecha la están utilizando para cercenar la proposición a proposición recorte a recorte haciendo valer y su mayoría absoluta los socialistas traemos

se posicione en relación a la reforma que el partido popular en exclusiva

jurisdicción de justicia universal no es mi intención sumir a esta cámara en un debate técnico sobre derecho internacional porque lo que pretendemos en realidad es un debate de principios

se oculta detrás de cada uno de los recortes de servicios derechos o libertades a los que el gobierno de rajoy

gracias presidenta es usted muy amable de cuestiones técnicas ajustes innecesarios

o cualquier otro eufemismo que les permita disfrazar como si fuera forzado todas esas decisiones que están tomando encantados de la vida así es señorías la verdad es que no sé de qué nos extrañamos cuando

siempre ha existido un programa oculto que lo vienen a ventilar y lo vienen a completar por la puerta de atrás se nos olvidan muchas veces los casos que han ocurrido hace muy poquito tiempo

un gobierno del partido popular con mentiras e insidias además de con mayoría absoluta llevó a españa a participar en una guerra injusta la guerra de iraq una decisión en la que el gobierno del pp eligió ir de la mano del amigo bush en vez de ir de la mano de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país que salimos a la calle para gritar no a la guerra

viene a cerrar ese círculo y se saca de la chistera una reforma legislativa que va a impedir entre otras cosas que nuestra tribunales puedan investigar el asesinato del cámara te televisión josé couso en iraq

no sea que el amigo se mosquee o que la investigación acabe salpicando algún ex presidente del que le pueda dar un dato más como por ejemplo que

que un gobierno del pp tiene problemas con la legalidad penal internacional y más concretamente con el principio de justicia universal se nos han olvidado ya los sudores fríos que recorrieron de arriba a abajo al gobierno de aznar con la detención de pinochet en londres gracias a la investigación abierta en españa

no nos acordamos de cómo el fiscal jefe de la audiencia nacional eduardo fungairiño que estaba

al sostener leo textualmente no existió genocidio en chile y aunque lo hubiera habido españa no tendría jurisdicción sobre el caso

y del señor rajoy es claramente una opción ideológica

cualquier aval de técnica jurídica no es otra cosa que excusas esta reforma es la parte del programa oculto del partido popular

por encima de la ciudadanía de sus derechos fundamentales y de las economías familiares

portavoz del grupo popular en el congreso de los diputados ha llegado a admitir que era necesario eliminar la justicia universal para evitar disputas inútiles que solo generan conflictos diplomáticos traducido al esperanto no permitas que la legalidad

todo hay que decirlo esta reforma viene precedida de las presiones ejercidas supuestamente por el gobierno de china para evitar que nuestro país

ez zaio entzuten indarra egiten ari da mesedez isiltasuna si es un tema muy interesante yo no sé por qué se ponen así señorías

por el gobierno de china para evitar que nuestro país siga adelante con las investigaciones relacionadas con el genocidio

vamos que volviendo a traducir al esperanto en esta reforma el veinte por ciento de la deuda pública española en manos chinas y las inversiones millónarias de las empresas en ese país ha pesado más que la defensa de los derechos humanos

recogemos los socialistas al igual que otros grupos de esta cámara

a la nueva realidad internacional la legislación referida al principio de jurisdicción universal de hecho ya en el año dos mil nueve el gobierno socialista realizó una reforma del artículo veintitrés

pero muchas son las diferencias operadas entre la modificación del dos mil nueve

llevar a cabo el gobierno del pp en primer lugar la reforma del dos mil nueve vino precedida de una reflexión general común y compartida la nueva realidad internacional que suponía por ejemplo

una legislación que tal y como se había venido a indicar por la jurisprudencia se nos había quedado algo obsoleta de esta manera

la anuló de establecer un principio de conexión con un interés nacional concretándolo en que la víctima fuera española o que en su caso presentó autor de los crímenes se encontraron en españa quiero recordar que en este punto estábamos de acuerdo

materializó y así consta en las actas de la sesión del veinticinco de junio del dos mil nueve celebrado en el congreso de los diputados

tribunales españoles en virtud del principio de jurisdicción universal sin embargo esta reforma del pp como digo y vuelvo a repetir

en primer lugar tal y como se ha denunciado ya el partido popular ha tratado de hacer esta reforma por la puerta de atrás

que supone tramitar la reforma sin pasar por el debate de las enmiendas en comisión y lo que es más preocupante

de estado y el consejo general del poder judicial que en los últimos tiempos y muy a menudo han venido sembrando dudas

en segundo lugar esta reforma impuesta por el pp solo ha encontrado el único consenso que es muy importante también esto del consenso pero teniendo en cuenta que es el de toda la oposición para emitir un rechazo conjunto y

en fin yo creo que no merece otra mención y por último lejos de ser una reforma que amplíe el catálogo de delitos perseguibles

especialmente los delitos y violaciones más graves de los derechos humanos sí señorías porque

por el partido socialista para simplemente recoger lo que los tribunales en su jurisprudencia nos venían diciendo eso que les hablaba del principio de conexión ahora le quieren ustedes imponer unos requisitos de perseguibilidad que hacen

justicia universal que hacen en la práctica inviable la posibilidad de que los jueces y tribunales españoles puedan proceder contra los presuntos autores de estos delitos execrables

se exige la residencia habitual en el caso de que el presunto autor no tenga nacionalidad española y además exigen el requisito que escapa a cualquier posibilidad de competencia del

de las autoridades españolas que es que se haya denegado una orden de extradición contra la persona contra la que se quiere proceder y si esta reforma es terrible en todo

de cómo es con la reforma del partido popular para perseguir los delitos de violencia de abuso sexual de mutilación genital femenina

tampoco será suficiente la nacionalidad española de la víctima o que resida habitualmente en españa ahora se necesita una querella

las mutilaciones genitales en españa efectuadas a una menor por sus padres o familiares

después de ser víctima de una violación a denunciar a un juzgado

por revisiones médicas de modo y manera que de esta manera exigiendo la interposición de una querella se está limitando se está perjudicando de manera absoluta la posibilidad de perseguir en españa este tipo de delitos y para colmo esa disposición adicional

supondrá que todos los procedimientos abiertos en españa en virtud de la jurisdicción internacional se sobresean de manera automática en resumen asesinato

vuelos de la cia sobreseídos genocidio en ruanda sobreseído

asesinatos de carmelo soria e ignacio ellacuría sobreseído casos de atropello de los derechos humanos a activistas saharauis sobreseído todo sobreseído todo

luego vendrán a reclamar declaraciones institucionales la vía está

estrangula en la práctica la posibilidad del ejercicio del principio de jurisdicción universal

más graves de los derechos humanos elimina la jurisdicción universal en pro de la impunidad de terribles crímenes contra la humanidad y es una muestra más

el partido popular siempre tiene un programa oculto que es mucho mejor dar o prevenir o prever aquello que hablábamos muchas veces de la profilaxis

señores del partido popular señorías el gobierno del partido popular está certificando la defunción de la justicia con mayúscula

a la defensa de los derechos humanos y debe ser poreso y por tanta certificación por la que están encantados y quieren privatizar el registro civil pero lo cierto ironías a parte es que

hemos presentado esta proposición no de ley para su trámite urgente siempre hemos entendido

decentes y por tanto también de las sociedades decentes

en cuyo tenor inicial pedíamos una cosa que consideramos que es muy importante no solamente manifestar rechazo oposición sino instar solicitar

no ha sido posible no sé por qué razón fundamentalmente porque es una medida

que nos parece muy importante bien como digo y voy terminando

no queremos decapitar no queremos que se permita decapitar a la justicia no queremos la desprotección universal de estos derechos

que van a desaparecer su protección va a desaparecer su protección judicial por lo menos en españa y por eso señorías en nombre de la decencia y sobre todo de la propia justicia les invitamos a que apoyen la enmienda transaccional que al final firmaremos entiendo

van a formar la mayoría de este parlamento muchas gracias eskerrik asko gallastegui andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa

básicamente de acuerdo con los planteamientos planteados por la señora gallastegui españa es un país donde el ejercicio de la jurisdicción universal ha permitido abrir procedimientos y dictar resoluciones que han contribuido

a luchar contra la impunidad y responder a la demanda de justicia de las víctimas de los crímenes más atroces gracias al

gracias a la reforma de la ley orgánica del poder judicial impulsada por la mayoría absoluta del partido popular esto

ha decidido liquidar la justicia universal habría que observar en primer lugar

se ha tramitado por la vía de urgencia en un pleno fraudulento sin debate ni argumentos favorables por el procedimiento de lectura

como el consejo de estado o el consejo general del poder judicial ha sido una monumental farsa lo que ha planteado el partido popular tanto por el fondo como por las formas una absoluta farsa en nuestra opinión la reforma vulnera la constitución española y sin duda

obedece a motivos extrajurídicos responde por lo tanto económicos a móviles políticos a móviles diplomáticos esta liquidación de la justicia universal esta farsa esta infamia debilita el estado de derecho contraviene el derecho internacional destroza los derechos humanos

de las víctimas las abandona y garantiza la impunidad de corruptos de mafiosos de genocidas y tiranos

lo que pretende lo que ha pretendido y lo que consigue llevar acabo el partido popular con su mayoría absoluta

ad hoc son obvias motivos diplomáticos motivos económicos motivos políticos españa o mejor dicho el gobierno del partido popular se vende a los jerarcas chinos y se vende también a otros países se vende

a mafiosos a genocidas y a tiranos suena duro pero esta es la realidad de los hechos españa se vende a los jerarcas chinos

contra varios ex mandatarios chinos por el genocidio en el tíbet

esta reforma absolutamente impresentable

pretende ahorrarles molestias a los tiranos chinos el gobierno de españa dice que nos interesa pero esto no nos interesa

nos interesaría a los ciudadanos españoles es fortalecer la democracia en china por ejemplo no que los chinos debiliten nuestra

esta reforma legal impulsada por el partido popular favorece la impunidad de genocidas y corruptos y deja a las víctimas

el pp alega que la existencia del tribunal penal internacional hace innecesaria la aplicación de la jurisdicción universal sin embargo

solo tres han sido interpuestas contra países que han ratificado el estatuto de roma falso pues lo que plantea el partido popular insisto su objetivo y lo que se pretende con esta reforma absolutamente

chinos ceder ante corruptos ceder

ceder ante genocidas gracias al partido popular se garantiza de este modo la impunidad de numerosos criminales y se desampara a víctimas habidas en el tíbet a víctimas habidas en guatemala a los familiares

a los familiares de carmelo soria a las víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos a decenas de saharauis a víctimas del holocausto

en ruanda a los familiares de ignacio ellacuría asesinado por el ejército salvadoreño a refugiados iraníes a víctimas del ejército iraquí a las niñas que son llevadas a sus países de origen en áfrica para practicarles la mutilación genital

todo el mundo otra vez está en contra de un nuevo disparate del partido popular todo el mundo está en contra de un nuevo disparate cometido por la mayoría del partido popular los profesionales del derecho

internacional las organizaciones de derechos humanos los propios fiscales de la audiencia nacional toda la oposición democrática del país está

de este fraude de esta farsa y de este disparate cometido por el partido popular en conclusión estamos ante una infamia

a los dictadores chinos una medida y una reforma que pretende nada más y nada menos que favorecer a corruptos a tiranos a criminales y a genocidas una medida que desampara a centenares de víctimas en definitiva una absoluta infamia inaceptable
para cualquier persona que se pueda considerar demócrata gracias eskerrik asko maneiro jauna

giza eskubideen urraketen biktimak asetzea iskanbilatsua baita egia y es que la proposición de ley que ayer ya

a establecer nuevas condiciones para el ejercicio de la justicia universal minimizando aún más su extensión vaciándola de contenido dejando en la más absoluta desprotección a víctimas de delitos

según amnistía internacional cualquier requisito impuesto ya sea territorial personal de nacionalidad de la víctima o del perpetrador es ya una limitación inaceptable de la justicia universal hablamos de crímenes que por su gravedad

merecen ser protegidos por la comunidad internacional tales como genocidio crímenes de lesa humanidad crímenes de guerra ejecuciones extrajudiciales o desaparición forzosa

el año dos mil nueve el congreso de los diputados ya había aprobado con apoyo de varios grupos que han sido mencionados por la señora gallastegui una primera restricción

aquellos delitos contra la humanidad cometidos en el exterior si existe algún vínculo de conexión relevante en españa este era el elemento principal

sirvió también para archivar casos de delitos de lesa humanidad tal y como fueron algunos referentes a bombardeos que israel había perpetrado contra palestina sin embargo ahora

aún más esos requisitos para que la justicia española pueda conocer de estos crímenes la audiencia nacional solo atenderá

en los que o bien el acusado sea español o aunque sea extranjero resida o se encuentre en españa con semejante restricción incluso aquel término más amplio de conexión relevante que se mencionaba en la reforma que se practicó el dos mil nueve parece incluso un salvavidas para algunas víctimas víctimas como josé couso tras el bombardeo de las tropas estadounidenses contra el hotel en el que se encontraba la prensa

el genocidio del tíbet perpetrado por china el genocidio del pueblo saharaui

casos que ahora quedarán desprotegidos que quedaran sobreseídos la iniciativa que se ha llevado al congreso y ayer al senado

que indica que son los tribunales de los estados quienes deben enjuiciar casos que les correspondan por legitimación territorial o personal y que será en el caso de que esos tribunales no puedan o no quieran operar no quieran

cuando las víctimas tendrán la posibilidad de exigir su tutela judicial efectiva ante los tribunales de otro estado o ante tribunales

desde esa concepción se establece más un régimen de conflicto de competencia entre jurisdicciones que un sistema que satisfaga el derecho de todas las víctimas a obtener

delitos graves pero delitos de consideración transfronteriza con delitos de derecho penal internacional se categorizan las víctimas

de la naturaleza de los delitos se elimina la iniciativa de los jueces de instrucción y de la acusación popular para impulsar estos procedimientos se impone el sobreseimiento de todas las causas lo cual supone una intromisión además retroactiva del poder legislativo en el judicial se ha empleado además un sistema de urgencia de lectura única para tramitarla

lo cual es una imagen de cómo opera la mayoría absoluta del partido popular en definitiva un escándalo que parece indicar que para el gobierno español lo verdaderamente molesto

y no los perpetradores decía al inicio que el estado español no le gusta la justicia universal no le gusta que tribunales de terceros países verifiquen situaciones graves de vulneración de derechos humanos en el estado español no le gusta que algún juez independiente

pueda iniciar un procedimiento de verificación de vulneraciones de estados amigos o aliados o que por ser demasiado poderosos no sea bueno desagradar

o algunos otros aliados menores sea israel sea marruecos una fuente de jaleos diplomáticos jaleos con poderosos miembros del consejo

no irritar la reforma perpetrada en cortes generales no es sino un acto de sumisión besterik ez eskerrik asko

non gertatu den eta egilearen eta biktimaren nazionalitatea kontutan hartu gabe el estatuto de roma de la corte penal internacional ratificado por españa afirma que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo

e intensificar la cooperación internacional para que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia el artículo veintitrés punto cuatro de la ley orgánica del poder judicial

no contemplaba restricciones ni limitaciones tales como la conexión con intereses españoles criterios de necesidad presencia del acusado en el territorio español

solo podía perseguirse los presuntos criminales si estos se encontraban físicamente en españa

sin explicar en qué consistía este vínculo y siempre y cuando en otro país competente o ante un tribunal internacional no se hubiera iniciado un procedimiento que supusiera una investigación o una persecución efectiva de los hechos y estas reformas o modificaciones en el citado artículo se hicieron motivadas

para que los tribunales del estado fueran más eficaces en la persecución de estos graves delitos

si no tenemos al responsable en nuestro territorio ni incluso hacer una investigación adecuada porque el delito no ha sido cometido en nuestro territorio se preguntaba una diputada del partido popular concluyendo al estado español no le sirve de nada

sobre los derechos de las víctimas abriendo vacíos jurídicos en su aplicación y se sentaba la base de la subsidiariedad de los tribunales y no la complementariedad

que hoy nos ocupa en su exposición de motivos ya deja claro que el principio de subsidiaridad ya no es suficiente y amparándose en los límites y exigencias propias del derecho internacional

los supuestos en que la jurisdicción española puede investigar y conocer delitos fuera del territorio del estado la exposición de motivos de esta reforma planteada por el partido popular

es decir los diputados del partido popular determinen qué delitos cometidos en el extranjero pueden ser perseguidos por la justicia española en qué casos y en qué condiciones

entiende que la apertura de los procedimientos debe condicionarse a la presentación de querella por el ministerio fiscal o la persona agraviada por el delito el partido político que propone esta reforma considera excepcional perseguir estos delitos cometidos fuera del estado en el que fueron cometidos y sin embargo no considera

o suficiente gravedad los crímenes así considerados internacionalmente y amplía las posibilidades para que estos crímenes queden impunes no se tiene en cuenta

generan responsabilidad individual penal independientemente del territorio en el que se cometa

de graves crímenes que independientemente del lugar de su comisión y de la nacionalidad de los autores o de las víctimas atentan contra la comunidad internacional en su conjunto estos crímenes tales como el genocidio

la comunidad internacional ha sido muy clara estos crímenes han de ser castigados y todo estado debe perseguir investigar y castigar o extraditar a sus responsables la proposición de ley del partido popular

que no solo pervierte el concepto de jurisdicción universal sino que prácticamente la hace desaparecer del ordenamiento jurídico y lo hace incorporando límites en su ejercicio

y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas este requisito es contrario al convenio de ginebra que también es parte de ese

de motivos como argumento para la propuesta de ley convenio que recoge que cada una de las partes contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido u ordenado cometer una cualquiera de las infracciones graves

ante los propios tribunales sea cual fuera su nacionalidad otro límite es el de las personas competentes para interponer recursos se exige para poder instar la actuación de los tribunales la presentación de querella por el ministerio fiscal

se establece asimismo el principio de subsidiaridad de los tribunales del estado respecto a la corte penal internacional y sobre los tribunales de los países donde puedan residir los autores de los delitos pero la exposición de motivos de la ley omite que la corte penal internacional es un tribunal permanente creado por los estados al que le han reconocido competencia no tiene competencia sobre otros países

que hoy se han citado sobre rusia china y estados unidos

introduce asimismo una disposición transitoria en la que se establece que a la entrada en vigor de la ley las causas que se encuentran en tramitación quedarán sobreseídas

es decir que quedará sobreseída la causa del tibet además de todos estos límites en el ejercicio real de la justicia universal esta reforma destaca por otro aspecto no menos importante y que aquí ya ha sido citado el de la forma

esta reforma este procedimiento elimina la necesidad de elaborar un anteproyecto de ley que en esta materia por estar regulada por tratados internaciones

comenzaba mi intervención con una pregunta por qué y para qué se realiza por el partido popular esta reforma de justicia universal

estaba perjudicando las relaciones políticas económicas y diplomáticas del estado con algunos países con estados unidos y con israel entre otros dos mil catorce se señala que la persecución penal de algunos antiguos jerarcas de china por crímenes contra la población del tibet está generando malestar con el gobierno chino

de todo ello se extrae la siguiente conclusión que la persecución internacional de estos crímenes tipificados y consensuados en el orden internacional son subsidiarios a la defensa de otros intereses no los de las víctimas de estos graves crímenes

muchas gracias señora presidenta pues como nos ha dicho la señora gallastegui repitiendo
el debate del congreso y del senado aquí no estamos hablando de derecho internacional sino de ideología

da igual el resto y punto y vale para todo nos habla del programa oculto del pp que siempre hablamos de la herencia del psoe

es que no pudimos cumplir ninguno de los planteamientos que íbamos a hacer precisamente por la herencia que dejaron ustedes

si usted me insiste en sacárselo se lo tendré que volver a repetir

que es el procedimiento el procedimiento ha sido lamentable el procedimiento del partido popular utilizando su mayoría absoluta utiliza un procedimiento

de ley en el que todos ustedes han tenido plazo para presentar enmiendas en el que se ha debatido al menos tres veces en el congreso

y les voy a recordar cuando hablan aquí del procedimiento y que faltan informes por lo visto el grupo popular en el congreso es el único grupo que no puede presentar proposiciones de ley todos los demás sí que pueden el grupo popular no en la reforma de dos mil nueve bien no nos den lecciones

que regulaba la justicia universal esta reforma se hizo mediante una enmienda a una ley ordinaria

y fue tal la chapuza que salió del congreso de los diputados un proyecto de ley

sin ningún informe de ningún tipo sin posibilidad de enmendar la enmienda esto es lo que hicieron ustedes gobernando ustedes y nos echan a nosotros nos dicen que hemos utilizado un procedimiento

hablamos del procedimiento pero esa fue la chapuza que hicieron ustedes y evidentemente nosotros lo apoyamos porque en fin de vez en cuando también nosotros si tenemos

pues si parece que al gobierno este tema le parece muy urgente y debe hacerlo pues estas cosas sentido de estado pues

cuando no está en el gobierno pero no nos hablen de procedimiento y menos desde el partido socialista

para ampliar los delitos perseguibles que no sé por qué ustedes se oponen

a que la jurisdicción de la justicia universal pueda juzgar delitos contra la mujer

e integridad sexual de los menores de edad y contra las corrupciones en transacciones económicas internacionales que es los delitos a los que se amplía en esta reforma la capacidad de perseguir desde tribunales españoles por actos cometidos en el extranjero no les he oído a ninguno de ustedes

a ampliar los delitos que pueden perseguir los jueces españoles y sin embargo parece que se oponen al segundo motivo de la reforma que es reforzar la seguridad jurídica es decir

porque para qué va a estar un juez instruyendo un juicio si no se va a juzgar nunca y nunca es nunca

porque lo saben que no se puede juzgar a nadie en rebeldía en estos casos y por lo tanto al que se le va a juzgar tiene que estar en este país si se le va a juzgar en españa tiene que estar aquí

de todos esos delitos que todos ustedes nos dicen que están pendientes están pendientes desde hace diez y quince años

pendientes porque no se van a resolver nunca porque no se van a juzgar nunca

y lo saben ustedes si la exigencia de que esté en españa no es nueva

desde la reforma que por cierto aprobaron ustedes sí sí sí sí claro sí en el año dos mil nueve sí porque no se puede juzgar en rebeldía a nadie

vamos a hablar de lo que nos gustaría que nos venga yo a la representante nacionalista

y rusia pero españa muchas gracias por reconocerle esa capacidad al gobierno de españa

en fin la corte penal internacional no tiene capacidad pero nosotros sí nosotros podemos juzgar a todo el mundo en todas partes y además hacer cumplir

por eso hasta la fecha y desde el año mil novecientos noventa y seis solo ha habido una condena

y que además decidió que sí se dejaba juzgar en españa

único juicio y única condena en más de veinte años de verdad han venido aquí a hablar de lo que les preocupan a ustedes las víctimas de estos delitos de verdad están hablando de justicia o están hablando de vamos a hacer mucho ruido porque nos da igual lo que ocurra

es para que se pueda juzgar y condenar lo que españa puede juzgar y condenar en base a los convenios internacionales señora gallastegui sí a los que firma españa

empezando por eso y es evidente que es excepcional

fuera de su país es evidente y es evidente que si la corte penal internacional está juzgando un delito pues no pinta nada ningún juez español haciendo lo mismo y cuando dicen ustedes y el requisito de que no se haya pedido la extradición

no se puede juzgar en otro país pues claro es lógico es lógico porque

cuando el país de origen no juzga o cuando no tiene capacidad de hacerlo y quién decide eso el tribunal supremo

el criterio de oportunidad que existe en casi todos los países de europa en esta materia

pero son ustedes son ustedes los que nos tienen que decir por qué el partido nacionalista vasco por qué el partido socialista de euskadi y por qué bildu

abusos sexuales acoso sexual en el caso de menores de edad por qué ustedes se oponen a ampliar los delitos contra la mujer

acoso violencia física violencia sexual incluidas las violaciones matrimonios forzosos abortos y esterilización forzosos por qué se oponen a ustedes a ampliar

porque todavía no les he oído que nos digan por qué nos decía la señora gallastegui en el caso de la mutilación genital femenina que es en lo único hoy perseguible a ver si la niña iba a ir no hace falta que vaya la niña lo sabe usted el fiscal también puede hacerlo

no puede denunciarlo está obligado con nuestra legislación a hacerlo está obligado a hacerlo por lo tanto

como se me está acabando el tiempo en esta primera intervención me parece muy bien que ustedes crean tanto en la justicia española y en los jueces españoles en la audiencia nacional que es otra de las cosas a las que se oponen ustedes no hay que sacarlo de la audiencia nacional hay que llevarlo al tribunal supremo que es lo que hace la reforma estoy encantado de que los partidos nacionalistas representados en esta cámara reivindiquen a la audiencia nacional

porque tenemos unos jueces fantásticos y maravillosos yo estoy de acuerdo con todos ustedes en que eso es así y por lo tanto pues quizás deberíamos de pensar

visto el reconocimiento que los partidos nacionalistas incluido bildu hacen de la capacidad el bien hacer y el bien juzgar de la audiencia nacional quizás deberíamos replantearlo

habido motivos interesantes y oposición a

creo que voy a hablar más despacio porque me va a dar tiempo a decir todo lo que tengo que decir primero en relación con el procedimiento como

está claro y creo que no hay ninguna duda la reforma del dos mil nueve amplió el catálogo de delitos perseguibles y enjuiciables en función del principio de jurisdicción universal volveremos al tema ese que decía el señor damborenea porque efectivamente

en la tramitación de esta proposición de ley de ustedes metimos algunas enmiendas

el acuerdo del convenio del consejo de roma de once de mayo del dos mil once sobre prevención

doméstica que se refiere a delitos de violencia psicológica acoso mutilación etcétera el problema es que la restricción procesal que ustedes están intentando da igual que haya un enunciado porque

recogidos en cuanto a la modificación operada sobre la ley de jurisdicción universal en el mandato del gobierno socialista

y es que yo puedo decirles a ustedes que vayan directamente al libro del congreso

un acuerdo del noventa por ciento del arco parlamentario y se recogió esa existencia jurisprudencial que luego hablaremos señora vaquero en cuanto al planteamiento que usted hacía

reculando de lo que ustedes aprobaron y le voy a leer además esa exigencia jurisprudencial del principio de conexión lo aprobó

de lectura única era un trámite efectivamente con un proyecto de ley que se presentó y se presentó una enmienda a ese proyecto de ley que regulaba de manera diferente la jurisdicción universal para cumplir con el principio de conexión

una enmienda y como usted sabe señor damborenea las enmiendas ni se informan por el consejo

es un trámite parlamentario que usted lo sabe perfectamente la señora vaquero

el partido nacionalista vasco no le gustaba esto de la supresión

era de supresión de parte de los conceptos integrantes y principales de la justicia universal

aquí yo creo que todos estábamos de acuerdo y para muestra un botón el señor olabarria quien fue el que participó de esa modificación legal decía qué problemas hay con establecer además decía

meter nuevos tipos y meter nuevos delitos contra la humanidad susceptibles de ser juzgados por otro país hay un tercer párrafo tan etéreo que es exactamente a lo que refería el señor

que en su contenido se establece la legitimidad de los tribunales españoles para presuntos responsables de crímenes

o que existan víctimas de nacionalidad española o que se pueda constatar algún

es decir el señor olabarria lo que venía a decir es que el principio de conexión es perfectamente exigible y que además esa

deja abierto el procedimiento para enjuiciar todo tipo de delitos y para prueba un botón porque de hecho cuando ustedes me refiero a usted señora vaquero el pnv ido contra a hacer sus manifestaciones en relación con la reforma del partido popular

meter enmiendas de supresión y solicitar el mantenimiento de la ley como actualmente está es decir poniendo en valor la modificación legal que se hizo en el dos mil nueve porque si ustedes no hubieran estado de acuerdo con eso

enmiendas de modificación en fin todo ese tipo de cosas que usted como parlamentario tiene que saber que existen en el trámite parlamentario

lo cierto y real en definitiva señorías es que hoy por hoy existen un montón de procedimientos abiertos justicia universal y que con esta ley con esta ley y de la manera más burda posible es decir con una disposición adicional van a quedar sobreseídos automáticamente y eso no es perjudicar gravemente la jurisdicción universal es decapitar a la jurisdicción universal y cuando yo hablo del programa oculto del pp lo digo porque yo

en el arco parlamentario en esta cámara y es leerme los programas electorales de los partidos y resulta que

hacen mención al término universal cuatro veces una

garantizar el acceso universal a las prestaciones sanitarias

no hablan de justicia universal para nada y si hablan de cosas universales para esto es mucho mejor que en fin

quedando con el acuerdo y con el rechazo de esta cámara

absoluto que se está perpetrando contra la justicia universal gracias eskerrik asko gallastegui andrea maneiro jaunak ez du hitzik hartu behar arzuaga jaunak

con este procedimiento o sea el utilizar este sistema de urgencia lectura única ha sido para resolver una chapuza que había anteriormente pues creo que han incidido y han ahondado y han profundizado aún más en esa chapuza

me habla por qué estamos en contra de que ustedes hayan incluido hayan extendido los delitos que ahora se podrían trabajar interpretándolos como jurisdicción

extienden los únicos delitos que no hacía falta que se extiendan los crímenes contra la humanidad que esta jurisdicción universal puede

la convención contra las desapariciones forzosas el convenio para la represión de actos ilícitos contra la navegación marítima el convenio para seguridad de la aviación civil y la convención para la protección

nucleares a la cual se puede añadir el convenio que instituye la corte penal internacional estos son los tratados que determinan cuáles son los delitos que se debieran de perseguir como

por algún tipo de obsesión han querido introducir otros delitos que es los que yo venía a llamar delitos transfronterizos que es verdad que tiene un

pero que tienen sus propios canales y que tienen sus propios procedimientos para ser verificados para ser investigados para ser perseguidos

tratados de extradición existe en europa precisamente una euroorden por la cual se puede trabajar esos delitos que tal vez a ustedes les obsesiona más y entre ellos los delitos de terrorismo es esto por lo cual ustedes en esto me imagino que no pondrán condiciones a los tribunales

de lesa humanidad contra la comunidad internacional en esos sí introducen un catálogo de requisitos exigen una lista de condiciones por qué se va a tramitar algo dice usted que no se puede juzgar por que están en rebeldía bueno usted tal vez conoce un ejemplo concreto

las personas perpetradoras que se están investigando y que se quieren perseguir están tramitando están solicitando

para poner a disposición de esa justicia que sí es universal a estos perpetradores usted dice el tribunal

acaso está esto mal la audiencia nacional activó solo en un caso scilingo un caso mejor que cero

instrumentos para que esto se pueda avanzar y para que esto se pueda profundizar

el sistema absolutamente no podía ser perfectible pero ustedes por lo que han optado es precisamente por hacerlo absolutamente irrelevante

es que las víctimas de perpetraciones de derechos de lesa humanidad delitos de lesa humanidad tengan herramientas

con los que poder confrontarse a esos perpetradores usted nuevamente dice que en esa mala interpretación que hacen del principio de subsidiariedad que en todo caso la corte internacional sustituya a los tribunales locales a los tribunales domésticos no es así los tribunales domésticos tienen la obligación de trabajar

el elemento principal que surge en estos casos entonces opera

internacional estoy convencido de que esta

mayoritario del partido popular es inconstitucional agrede compromisos convencionales que tiene asumidos el estado español y que por lo tanto forman parte del acervo constitucional y forman parte están integrados son vinculantes están traspuestos dentro de la legislación del estado español

quienes estén legitimados para hacerlo tendrán que valorarlo en este sentido decir que si bien tengo la consideración de que es inconstitucional las mayorías tanto en el parlamento o en el senado como en el tribunal constitucional son caprichosas esperemos que si sucede este

no se vea nuevamente abusado por una mayoría esta vez

bai mila esker presidente andrea eta labur labur en contestación a la representante del partido socialista sobre el recurso de inconstitucionalidad

no negamos esa posibilidad ni estamos en contra lo único que entendemos es que nosotros desde este parlamento como electos

parlamento no somos quienes para decirles a los miembros de otro parlamento

los grupos que aquí estamos representados tenemos mayoría suficiente para representar a los cincuenta diputados que son necesarios para poder presentar este recurso de inconstitucionalidad el representante del partido popular señor damborenea entiendo que ha intentado desviar el debate de fondo nosotros no nos oponemos a que se amplíen

perseguibles lo que nos oponemos es a las limitaciones que se establecen y que se plantean para que estos crímenes y sobre todo los anteriores sean perseguibles si se cometen fuera del estado español con la interpretación

porque se podría eliminar totalmente ya que carece de eficacia según le hemos oído decir porque total para juzgar únicamente a un dictador

no era necesario iniciar estos trámites lo triste es que y lamentablemente el problema que enfrenta a los estados en base a este principio de justicia universal no es precisamente el múltiple intento que tienen todos de juzgar a los responsables de los crímenes de derecho internacional sino más bien todo lo contrario

en su mayoría como ocurre en este caso con el gobierno de china

a la reforma del dos mil nueve yo creo que desde algún grupo se ha leído lo que se dijo

pero ha leído parte del diario de sesiones porque en toda esta reforma de la ley de oficina judicial

y en el senado se presentaron enmiendas y se acordaron cosas diferentes a lo que se había acordado en el congreso

del partido nacionalista vasco en el senado dice que

se amplía el apartado al de lesa humanidad y que con eso estamos de acuerdo

aunque sus socios del proyecto los señores del partido socialista han logrado persuadirles de que desaparezca y lo han hecho mediante otra transacción conjunta

que a todas luces desvirtúan y limitan el alcance de este principio que dice consagrarse de jurisdicción universal en lo referido a determinados delitos

dice desde la perspectiva vamos a votar que sí salvo

del que ya anuncio señora presidenta que efectivamente vamos a pedir votación separada por entender que la reducción del ámbito subjetivo de actuación de los jueces españoles en relación con los delitos de lesa humanidad

que se ha producido en el senado no tiene sentido por lo tanto el partido nacionalista vasco no votó a favor de esa reforma que ustedes y el partido popular consensuaron mila esker

muchas gracias señora presidenta señora gallastegui ya sé

que el grupo popular en el congreso hubiera planteado esta reforma mediante una enmienda a la reforma de la oficina judicial por ejemplo

que es lo que hicieron ustedes a una ley ordinaria

imagínese lo que nos hubiera dicho usted hoy si el partido popular hubiera hecho lo mismo que hicieron ustedes oiga y con mayoría

me habla del programa oculto me sigue hablando del programa oculto pues sí nosotros nunca pensábamos que íbamos a tener que salvar la sanidad universal y gratuita para todos los españoles

o la educación universal y gratuita para los españoles no pensábamos que íbamos a tener que llevar eso en el programa no lo pensábamos les creímos un poco pero claro es lo que hemos tenido que hacer estos dos años

que enseguida verá cómo además resolvemos otros problemas que también crearon pero volviendo al tema nosotros no hemos planteado esta reforma para resolver una chapuza

lo que se hizo en la reforma del partido socialista en el año dos mil nueve intentaba solucionar

por ejemplo que no se le puede juzgar a nadie si no está en españa es que eso ya está eso ya está hoy vigente y eso sí que lo aprobó el partido nacionalista vasco y firmó la enmienda con el partido socialista en el congreso de los diputados así que ahora no me vengan a mí con que es que nosotros sí nosotros no no ustedes lo firmaron y claro

ampliar que la jurisdicción española pueda perseguir fuera de españa

porque es que en la reforma del dos mil nueve se le olvidó a alguien y se le olvidó metió la ablación sí pero todos estos no estos no y nosotros lo que hemos propuesto es ampliarlo a todos esos no sé

de ampliar los delitos perseguibles por los tribunales españoles será a lo mejor es quizás sea

las víctimas tienen que tener herramientas pero herramientas útiles o se trata de engañar a las víctimas claro

si las herramientas que tenemos no sirven para juzgar y no se juzga a nadie en estos veinte años

y porque estaba aquí y dio el permiso para juzgarle eso es una herramienta válida para una víctima

y nunca se va a juzgar a nadie es una herramienta útil sirve de algo yo creo que es mejor no engañarles a las víctimas ahora quizás como decía ya que se ha citado un fiscal general del estado le voy a citar yo a la señora gallastegui a otro que

la justicia universal no puede convertirse en un juguete en manos de personas que buscan protagonismo y a lo mejor tengo que añadir yo y que además no les preocupa la efectividad de esa justicia a nosotros como sí nos preocupa

los delitos perseguibles y que sean juzgados es por lo que nosotros sí que apoyamos esa reforma muchas gracias eskerrik asko damborenea jauna

lehendakari señorías buenos días el veintiuno de febrero nuestro grupo el grupo parlamentario socialista planteó una interpelación al lehendakari a cerca de qué propósitos tenía en relación a llevar a cabo acciones para completar

el lehendakari entonces desgranó toda una serie de gestiones

por otra parte en el pleno del día seis la consejera de desarrollo económico la señora tapia también hablaba de la importancia que tenía el diálogo social como herramienta de trabajo para contar con un nuevo marco estable de relaciones laborales y de negociación colectiva la verdad es que aquí a todo el mundo se le escucha hablar en defensa del diálogo social en defensa de la negociación colectiva pero lo cierto es que

no las vemos por ningún lado de manera que esa es la razón por la que traemos hoy como consecuencia de aquella interpelación traemos esta moción moción que dice

convocando con carácter inmediato la mesa de diálogo social

permitiendo desde el máximo acuerdo posible llevar adelante los objetivos fijados en el plan de reactivación económica y empleo y estudiar las posibilidades de su complementación y refuerzo

digamos el carácter imperativo de nuestra moción por qué

de un foro de diálogo permanente en el ámbito de lo socio laboral nosotros creemos que eso es realmente así que es fundamental y también coincidimos en otra cosa que la defensa del marco propio de relaciones laborales es la defensa de la negociación colectiva también coincidimos en eso

vemos que por una parte y luego cuando hagamos el análisis de las diferentes enmiendas de los grupos parlamentarios veremos cómo está situado la posición de las líneas vemos que efectivamente esto termina por no concretarse no se concreta sabemos porqué porque

y nosotros negamos la mayor el derecho a la negociación colectiva no constituye en modo alguno obligación para nadie de negociar es decir el que no quiere negociar no negocia pero el derecho de los que sí quieren negociar debe de promoverse debe alentarse y debe facilitarse cosa que el gobierno en lo que estamos viendo no se hace

es por su sujeción al plan de empleo y reactivación económica que el partido nacionalista y el partido socialista suscribió el año pasado en el que se decía claramente que

un impulso a la negociación colectiva por parte del gobierno vasco de las iniciativas necesarias al objeto de que patronal y sindicatos alcancen acuerdos sobre la negociación colectiva en euskadi

entre los principios compartidos se decía la reactivación económica y la generación de empleo constituyen la máxima prioridad de las instituciones vascas y de los partidos que suscribimos el presente acuerdo

económicamente fuerte y socialmente cohesionada implican que el empleo sea una exigencia del conjunto de la sociedad vasca y por lo tanto su impulso y mantenimiento deben ser también un compromiso de los agentes económicos y sociales es decir

que el desarrollo el destinatario urgente de la moción pero también de ese plan económico y de empleo es en la mesa de diálogo social donde agentes económicos y sociales deben de participar para establecer cómo se van a gestionar esos seis mil quinientos millónes que para el próximo trienio se plantean en dicho programa

que el gobierno sí reconoce señor lehendakari que la necesidad de diálogo social existe que se compromete a que este año sea finalmente

quiere decir que está asumiendo que es una asignatura pendiente y como tal asignatura pendiente nosotros décimos mire señor lehendakari grupos de este parlamento creemos esa mesa se tiene que convocar como digo con carácter permanente por muchas razones pero por lo menos para hacer realidad este acuerdo que hemos suscrito y para que

puedan complementarlo puedan implementarlo y puedan decidir consuno con el gobierno los mejores fines y destinos para esas partidas y ahora en el análisis de las diferentes enmiendas que nos han presentado los grupos

nos viene a decir como decía cuál es la disposición de las líneas por una parte tenemos a bildu que está en la posición efectivamente de que no se convoque nada mientras no estén todos y mientras no estén todos no hay

eso es coincidente con las tesis que los sindicatos

vienen planteando y luego le pide otra cosa más al gobierno que elabore nada más y nada menos que todo un modelo socioeconómico nosotros no nos atrevemos a tanto a decirle al gobierno que presente o que formule

nosotros solo le pedimos que convoque esa mesa de diálogo social aunque sea solo a efectos de cumplimiento de los acuerdos que tenemos con nosotros y partido nacionalista vasco

viene a decir lo mismo es decir no que el diálogo social se haga en este ejercicio sino cuando vuestras mercedes sindicales lo decidan y nosotros no estamos por esa labor sí sí lo dicen lo vienen a decir en su enmienda y es cuando existan las condiciones pero es que esas condiciones no son meteorológicas que pueden ser o no ser dependen de una voluntad y es más si están pensando que tras el proceso electoral sindical que va a haber este año en el que van a concurrir cuatrocientos cincuenta mil trabajadores

si eso va a suponer una revisión crítica de esa estrategia que va a dar lugar a cambios se equivoca porque lo único que va a ocurrir como se está demostrando ya en el ejercicio pasado es que las elecciones sindicales

confirmar cuál es la correlación de fuerzas que sistemáticamente en el ámbito sindical como en el político se reproduce de forma permanente por lo tanto no va a haber cambios

el gobierno va a dejar a merced de esa eventualidad la constitución de la mesa y va a llevar adelante todo lo que tiene que ver con la concertación y el diálogo social pues aquí hay una contradicción importante porque el gobierno decía que en este año sería

si las centrales sindicales remisas a hacerlo van a cambiar de postura por lo tanto

si va a ser esa convocatoria cuando realmente todo el mundo esté de acuerdo o si en este ejercicio se va a hacer nosotros lo que pedimos es que no perdamos el tiempo

al menos para darle sentido y contenido al plan económico de reactivación del empleo que como digo tiene esos destinatarios como finalidad no hemos hecho

que aquí en este punto el partido socialista se queda solo y no nos importa en la

que lo están pidiendo también sectores importantes del empresariado y sectores importantes del mundo sindical esa es nuestra posición

egon behar da por eso décimos que la mesa de diálogo social necesita de la participación de la mayoría de cada una de las partes para ser efectiva

en caso de que no se den las condiciones y garantías suficientes para la participación de la mayoría de la representación de cualquiera de las partes entendemos que no se debería

hace unos meses en un debate semejante nosotros presentábamos una enmienda que podría reproducirse en el día de hoy que pienso que era bastante constructiva y que

a la patronal y a los sindicatos vascos a profundizar con la máxima lealtad y responsabilidad en el diálogo social y la negociación y al gobierno a propiciar un entorno favorecedor del necesario proceso negociador

la máxima cohesión social evitar la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores y favorecer la actividad de euskadi en esa enmienda planteada ya digo hace unos meses en un debate semejante también proponíamos instar y decíamos especialmente a los empresarios a actuar con responsabilidad y altura de miras a no dar por finalizado el proceso denegociación a volver a intentar el acuerdo con los trabajadores y a no abusar del nuevo poder negociador que la injusta reforma laboral del gobierno de españa

que definía como injusta la reforma laboral del gobierno de españa además de inútil ahí están los datos que quizás luego me dé tiempo a dar quizás sino

y a la necesidad de defender el diálogo y la negociación entre los empresarios y los trabajadores con los objetivos ya digo de defender la cohesión social evitar la precarización

de euskadi en el debate que tuvimos la semana pasada con motivo de la comparecencia del gobierno para explicar su posición ante el nuevo modelo de relaciones laborales

varios meses resaltamos la importancia del papel de los sindicatos la importancia de que actúen con responsabilidad la importancia de que abandonen posturas de confrontación y apuesten por la negociación la importancia de la negociación y la confianza mutua entre sindicatos y empresarios

para todas las partes incluyendo condiciones dignas y estables para los trabajadores y por lo tanto la importancia del diálogo y la concertación social

del diálogo social y la convocatoria de la mesa de diálogo social tal como propone el grupo socialista especialmente ahora cuando nos amenaza la vigente reforma porque tal y como decía el señor itxaso en su interpelación la alternativa al diálogo social no es otra cosa que la imposición pura y dura de los poderes económicos los trabajadores estamos de acuerdo con esta afirmación y por tanto de acuerdo en lo que se propone en la primera parte de la iniciativa y de acuerdo también

donde quiso poner en valor el diálogo social y la concertación social ahora se trataría de pasar

el señor itxaso por tanto de acuerdo con que se convoque la mesa de diálogo social para implicar a los agentes económicos y sociales en las medidas de empleo

otra cosa es que estemos de acuerdo con las medidas pactadas entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi entre ellas el plan de reactivación económica y empleo ahí digamos que nosotros no entramos nos mantenemos al margen somos críticos quizás podría haber sido posible que el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi

pero finalmente no ha sido posible entiendo yo que por la exigencia del grupo socialista de que se convoque la mesa de diálogo social ya sin esperar

enmienda que creo que es la enmienda más razonable como suele ser habitual en estos debates por otro lado nosotros proponíamos instar al gobierno vasco a defender una política económica para la creación de empleo estable digno y de calidad y a que escuche y atienda las reivindicaciones de los grupos parlamentarios expresadas en sede parlamentaria

instar al gobierno vasco a dar cuenta periódicamente en el parlamento vasco de los resultados que obtienen sus políticas sus planes sus programas para la creación de empleo y la reactivación económica porque en demasiadas ocasiones da la sensación

invierten habitualmente más en propaganda que en empleo

que en políticas justas para salir de la crisis económica por eso nos parecía importante que el gobierno cuenta de los resultados realmente obtenidos por esa multitud de planes programas etcétera que se anuncian permanentemente en distintas

y proponemos en el tercer punto instar al gobierno vasco a concretar su anunciada voluntad de concertación con agentes económicos y sociales convocando la mesa de diálogo

lo cierto es que nos encontramos en un escenario complicado e inestable que puede dar lugar a situaciones injustas para los trabajadores y

y tendido y se señaló con acierto la necesidad

pero en este punto es fundamental recordar que es imposible que la empresa sea competitiva sin tener empleados plenamente identificados con la empresa

involucrados en el proyecto empresarial partícipes e informados y con unas condiciones laborales dignas y estables de hecho los países más competitivos son aquellos que defienden y garantizan los derechos laborales de los trabajadores cosa que en demasiadas ocasiones

una empresa que quiera ser competitiva deberá adecuarse a la realidad del mercado innovar competir renovarse modernizarse observar y aprender introducir nuevas tecnologías introducir mejoras en la productividad y también cierta flexibilidad pero sin que ello suponga la aplicación

de las condiciones laborales y todo ello dentro de un marco estable y justo garantizado por los poderes públicos tratar de competir a base de precarizar

es ineficaz e inútil no nos engañemos por lo tanto y que las empresas no se engañen sin estabilidad en las relaciones laborales las empresas no podrán ser competitivas con una plantilla cuyos derechos laborales se vean mermados

las empresas no podrán ser competitivas con una plantilla injustamente tratada las empresas no podrán ser competitivas y a todos nos interesa que las empresas sean más competitivas y a todos nos interesa que los trabajadores no vean sus condiciones precarizadas a las propias empresas por eso hace meses llevábamos a los empresarios a la responsabilidad y a no abusar del poder que la injusta reforma laboral les otorga

en el interés general de los ciudadanos y en los derechos laborales de los trabajadores dado que una precarización de las condiciones laborales y en concreto una bajada masiva de su salarios como está ocurriendo en los últimos tiempos no solo sería algo injusto

y la cohesión social y nos lleva a una sociedad empobrecida algo que por cierto está ocurriendo en los últimos meses estamos llegando a esa situación de sociedad

los trabajadores con peores o con menos derechos laborales y sociales

de primera magnitud de hecho una bajada generalizada de sueldos sería la puntilla

traería consigo una menor recaudación y caerían aún más las cotizaciones a la seguridad social con el consiguiente riesgo para el mantenimiento de un sistema público de pensiones por ello les pedíamos y les pedimos que actúen de manera

negocien con los trabajadores y no abusen de su poder y a los sindicatos también que actúen con responsabilidad lo dijimos también la semana pasada que opten por la negociación porque interesa y porque interesa también

que se modernicen que no olviden por supuesto cuál es su misión fundamental defender los derechos laborales de los trabajadores pero que opten por la

que no hagan un discurso del siglo pasado que actualicen su discurso y negocien que hagan valer su trabajo que hagan valer sus posiciones es indispensable

y por la negociación en fin en nuestra opinión es fundamental mantener la negociación colectiva iniciar la negociación colectiva convocar de diálogo social tanto los sindicatos como los empresarios les interesa a todas las partes interesa a toda la sociedad interesa a todos los ciudadanos en fin ahí está por lo tanto nuestra enmienda no ha sido posible efectivamente llegar a una transaccional pero no vamos a permitir que el señor itxaso se quede solo y aunque no estamos de acuerdo o digamos que no es asunto nuestro la segunda parte de su proposición no de ley puesto que él en valor o ha reforzado o ha resaltado la necesidad de convocar la mesa del diálogo social pues nosotros finalmente vamos a votar esa iniciativa de esa forma el señor itxaso no podrá decir que se ha quedado solo

señor itxaso que la convocatoria de la mesa de diálogo social servirá para complementar y reforzar las políticas de empleo y de impulso a la actividad económica puede estar seguro que si la mera convocatoria de la mesa pudiera impulsar la actividad económica aunque fuera de forma mínima dicha mesa hubiera sido convocada hace mucho tiempo

la última vez que debatimos sobre esta cuestión repito el pasado octubre que no se dan los condicionantes para convocarla los sindicatos entienden que es prioritario y previo a la convocatoria de la mesa de diálogo social solucionar

la semana pasada por lo tanto con estas condiciones de salida qué sentido tiene convocar la mesa de diálogo social

eta errespetatu akordioen bila compartimos la necesidad de llegar a acuerdos creemos imprescindible

de la falta de empleo y de las nefastas consecuencias de la reforma laboral

puede ser uno de los foros aunque no el único en el que se puede tratar la problemática laboral porque a la misma son invitadas patronal sindicatos administración y agentes económicos y sociales reiteramos la necesidad de diálogo de todos empresarios y los diferentes agentes económicos y sociales todos remando en la misma dirección denon esfortzua behar dugu lan egoera honi buelta emateko

elkarrizketa ez dadin hankamotz hasi compartirá con nosotros que lo importante es avanzar

entre los distintos agentes crear el marco de confianza que nos permita llegar a acuerdos y mejorar la situación actual se haga en el marco de la mesa de diálogo social

entre trabajadores patronal administración y agentes sociales y económicos se llame insisto mesa de diálogo social o de cualquier otra forma estamos de acuerdo en que se convoque la mesa y máxime cuando es una petición aprobada por mayoría en esta cámara

previamente existan los condicionantes que permitan llegar a acuerdos en beneficio del empleo como usted decía y de la actividad económica porque solo de esa forma cuando existan las condiciones previas será posible convocar la mesa de diálogo social para su verdadera función llegar a acuerdos en el ámbito sociolaboral

está trabajando con los representantes empresariales y con los representantes sindicales que han querido sentarse a dialogar con el gobierno para crear las condiciones de confianza mínimas que permitan la máxima eficacia y eficiencia de la mesa de diálogo social ayer mismo

señalaba que el reto de este año y usted también ha hecho referencia a la misma señor itxaso es

no creemos en la política de vetos participar en la mesa es voluntario pero aquellos agentes que deciden libremente no participar no pueden condicionar a los que libremente también han optado por sentarse a dialogar a intentar llegar a acuerdos

sindicatos y agentes económicos y sociales para buscar acuerdos que desbloqueen la actual situación laboral en euskadi y el gobierno está dispuesto a seguir intermediando a fin de crear las condiciones y clima necesario para que las partes puedan llegar a acuerdos a avanzar abogamos por el diálogo

o en cualquier otro foro y apostamos por seguir esforzándonos para que todos los agentes se puedan sentar y acordar unos mínimos

decidan sentarse todos juntos y en este momento el bloqueo de la negociación colectiva y la situación de las relaciones laborales dificultan

estamos convencidos que con el trabajo y esfuerzo que están realizando el gobierno patronal y algunos sindicatos los que han decidido reunirse

pronto insisto podremos contar con una convocatoria de la mesa de diálogo social

egun on guztioi bien señor itxaso aquí estamos otra vez hablando de la mesa de diálogo social yo de verdad que a mí no me importa hablar por lo que supone de la trascendencia del tema de la creación de empleo pero de verdad que esto parece el día de la marmota

este debate se reitera una y otra vez la constancia suele ser buena compañera de viaje la persistencia no tanto pero lo suyo y se lo digo con todo el respeto señor itxaso es que ya no es ni constancia ni persistencia empieza a ser una obsesión

hemos debatido la convocatoria de la mesa de diálogo social en muchas ocasiones

los tratamos en el pleno pasado que estuvimos hablando de empleo en una comparecencia destinada a este asunto y por eso yo

en todas las ocasiones y ahora lo vamos a reiterar que ha venido el asunto a esta cámara que estamos totalmente de acuerdo en que siempre es importante la negociación la concertación el acuerdo entre los agentes económicos y sociales pero si siempre es importante en los tiempos y en la coyuntura económica en la que estamos viviendo lo es aun más y es cierto y usted

los datos del empleo en euskadi no están siendo

para las políticas de empleo pero hombre yo creo que eso exige medidas

y a este desempleo hay que unir es verdad que las relaciones entre los representantes de los trabajadores y los empresarios pues no pasan por sus mejores momentos

es más imprescindible que nunca redoblar los esfuerzos para encontrar puntos de encuentro

puedan contribuir a relanzar euskadi a la incentivación de la creación de empleo y a llegar a acuerdos ya como le decía lo dijimos en el pleno de la semana pasada estamos

de negociación de las relaciones laborales y es necesario dotar al mercado laboral de una mayor movilidad debemos volver a crecer

y para ello es necesario poner en marcha todos todos los instrumentos precisos es preciso en primer lugar

es necesario que el gobierno vasco sea valiente que tome

cuando se anuncia el nuevo plan de empleo que fue aprobado a finales de enero dijimos que lo importante siendo importante la presentación del plan lo importante del plan es que se cumpla

el anterior plan se quedó lejos de cumplir sus objetivos lo importante de este es que los cumpla

es necesario cambiar las políticas porque como decía el anterior no lo cumplió se establecía que se iban a crear una serie de empresas pero lejos de pasar eso lo que sucedió es que se

por lo tanto como le decía los planes del gobierno no están para rellenar folios no están para hacer presentaciones o ruedas de prensa sino para cumplir objetivos y para crear las condiciones necesarias dirigidas a la creación de empleo y el impulso empresarial

es fundamental y es verdad que la mesa de diálogo no es único instrumento en la que se puedan llegar a este tipo de acuerdos

hay otros canales para confrontación de proyectos de ideas de iniciativas pero por qué no como usted ha dicho la mesa es uno de ellos

más allá de esto es momento de trabajar entre todos de aunar esfuerzos para bandear esta difícil coyuntura económica y paliar las consecuencias nosotros siempre hemos votado favorablemente a esta iniciativa cuando se sustanció en comisión cuando se sustanció en pleno

tómemelo a broma señor itxaso aunque le amenacé en su día con que si la volvía a presentar no le volvía a votar le voy a volver a votar a favor de la convocatoria de la mesa de diálogo

el gobierno debe convocarla y debe convocarla independientemente de quien vaya es verdad como ha dicho la señora arregi que la asistencia es libre que queda a criterio de los participantes si quieren ir o no

pero lo que no se puede pretender lo que es inadmisible es que quien no va lo que quiere es que no se constituya la mesa que no se reúna la mesa no se puede aceptar esa intención de boicotear las reuniones tienen

no se puede dejar en manos de una de las partes la posibilidad de si se celebra o no se celebra la reunión porque usted lo decía señora arregi ir o no es decisión de los participantes pero convocarla es decisión del gobierno vasco

hacerlo debe convocarlo y quien no quiera asistir que no asista que no asista porque si no se hace así si no se convoca porque hay agentes sindicales que no van a querer asistir lo que se está haciendo es ceder al chantaje de esas centrales sindicales se está siguiendo su estrategia cuando se sustanció la interpelación usted señor itxaso hablaba de la actuación legítima de los sindicatos

no sé si será legítima pero creo que no responde a lo que debe de ser su función natural

que no sentándose a confrontar ideas aunque no se esté de acuerdo no es una buena manera de defender los intereses de los trabajadores porque no es beneficioso para ellos

que le demos por muchas iniciativas que usted presentará y le seguiremos apoyando desde el grupo popular creo que no es cuestión de lo que digamos aquí o de lo que acordemos aquí creo que a quien le corresponde es al gobierno vasco creo que es el gobierno vasco el que debe hacerlo debe de convocar la mesa de diálogo y como decía si quieren

no acudir pues no acudirán pero eso

de quienes arrogados en posturas maximalistas no sé cuales son los derechos que quieren defender nada más muchas gracias eskerrik asko

y por lo tanto estaremos en este tema lo que sea necesario porque

nos empecinamos pero en algo que resulta que todo el mundo comparte que es la importancia del diálogo social la negociación colectiva una cosa es lo que décimos y otra cosa es lo que se hace nosotros también estamos convencidos de que el gobierno y el señor lehendakari está convencido de la importancia que tiene todo esto que planteamos

en fin elementos atmosféricos son voluntades concretas y estrategias sindicales que sí señora llanos claro que son legítimas nosotros no las compartimos abiertamente pero es que el ejercicio de la libertad sindical y de otras libertades públicas toda esa panoplia de posibilidades lo que nosotros décimos es que a los fines a los intereses de euskadi y de los trabajadores de las empresas de la economía del empleo esas estrategias realmente son contraproducentes lo que décimos es que realmente el gobierno

no puede seguir manteniéndose al pairo esperando que cambie la voluntad de esas centrales sindicales

hay una voluntad una voluntad que el gobierno plantea eso es a lo que nosotros nos referimos aquí se ha hablado efectivamente

que tuvieron lugar sobre la propuesta de adegi es curioso que el sindicato mayoritario ela que habla de pactos de empresa y que tiene su mayor presencia en gipuzkoa no se ponga de acuerdo con adegi que también habla de eso

pero eso no va a ocurrir porque aquí de lo que estamos hablando es de que se invocan muchas cosas se apelan muchas cosas pero luego la inacción es lo que aparece le agradezco señor maneiro

efectivamente ustedes no suscribieron ese acuerdo pueden tener razonables motivos de objeción

pero nosotros hacíamos dos reflexiones una la importancia general el propósito general que tiene una mesa de diálogo social la concertación el diálogo como propósito general y otro que si aun teniendo esa importancia

no se auspicia no se promueve no se dinamiza al menos que se hiciera por mor de unos acuerdos que nuestro grupo y el grupo de gobierno tiene formalizados aunque no fuera más que por eso pero nosotros creemos que más allá de lo que es el desarrollo de ese plan

por eso traemos esa moción además por otras razones que usted señor maneiro también ha mencionado y a la señora zulaika decirle que efectivamente nosotros no estamos de acuerdo

pueda impedir el ejercicio del derecho de las minorías sindicales claro que estamos en desacuerdo pensar que

eso da carta de naturaleza o patente de corso para arrumbar orillar

de que otras representaciones sindicales no tan importantes pero representaciones sindicales al fin quieren llevar acabo

que auspicien que potencien porque de la negociación colectiva no necesariamente estamos afirmando que vayan a salir los convenios los convenios surgirán si efectivamente se concluye

la negociación colectiva puede no dar lugar a los convenios por eso creemos que también hay

la confrontación creemos que no es incompatible con el diálogo al contrario

forma parte intrínseca de lo que es la dialéctica es decir qué se confronta

y harto sospechoso es que alguien hable de confrontación y no quiera llevar al terreno de juego de la dialéctica la confrontación

sino que todo lo más se esconden detrás de una pancarta por eso nosotros

una y otra vez porque creemos que es fundamental para el desarrollo de la economía del empleo y sobre todo en estas coyunturas

en estos días los datos son realmente preocupantes

será reiterativo muchos temas lo son pero también es una asignatura pendiente y mientras lo sea nosotros lo seguiremos trayendo nada más eskerrik asko itxaso jauna

entendemos que es importante el diálogo social pero que es muy importante

qué partes estén representadas en esa mesa de diálogo social y está claro que la mayoría sindical de este país

no está por la labor incluso aquellos que estuvieron en su día tampoco hoy lo ven muy claro hago referencia a ugt y en este sentido sí que voy a leer

email que manda la unidad de ugt a los trabajadores de lanbide

ha apostado siempre por la negociación hemos necesitado tiempo para convencernos de que el diálogo está muy difícil ante esta situación y por respeto a las asambleas en las que ha habido posiciones y propuestas muy variadas

para participar en las movilizaciones es decir ugt hoy en día tampoco

clara la entrada en esa mesa de diálogo social y aquí se ha hablado también mucho respecto a vetos respecto a la parte sindical

a cuál es la actitud de la parte que representa a la parte empresarial de confebask una actitud que ha dejado muy clara que

llevar a cabo todas las posibilidades que le permiten la reforma laboral por lo tanto diálogo sí pero un monólogo no que es lo que se daría

esaten zuen horrela hurrengo galderari ve posible recuperar en los próximos meses cuando la economía mejore el diálogo social entre empresarios y sindicatos y el señor lehendakari respondía no está en función solo de que escampe la crisis sino de las estrategias de las organizaciones empresariales y los sindicatos

no escenificamos las reuniones el gobierno no se está moviendo y ahora viene lo más importante yo me he fijado en el año dos mil catorce como un año en el que alcanzar un diálogo social vamos a ver si vamos empastando por lo menos una mayoría de agentes más allá de la representatividad que tengan

guretzat iruzurra soilik ez dena qué es eso qué va a ser eso una comparsa

de la sociedad vasca besterik gabe eskerrik asko

sí gracias presidenta señor itxaso

hay que convencer a otros treinta y cinco para que voten a favor de ella y pueda salir adelante no parece que vaya a ser así pero en todo caso yo creo que al menos en nuestro

es hacer esa llamada a la convocatoria de la mesa de diálogo social y bueno pues básicamente por eso nosotros apoyamos esta iniciativa

en una especie de guerra parlamentaria en la que cada grupo político tratara de defender sus posiciones más o menos históricas

o tampoco entre una especie de guerra entre sindicatos y las empresas creo que teniendo en cuenta los datos objetivos que sufrimos deberíamos ser capaces de dar

para salvar la situación y dar la vuelta a esta situación digo que ahí están los datos algunos de los datos que están planteados en la justificación de esta iniciativa las ciento setenta y cinco mil personas que en euskadi están en situación de desempleo

pero hay otros datos ciertamente preocupantes que algunos gobiernos y algunos partidos políticos tratan de ocultar cada vez que debatimos de esta cuestión y especialmente la calidad del empleo que se crea

tanto en euskadi como en el conjunto de españa estamos sufriendo claramente una precarización del empleo estamos sufriendo un empleo de mala calidad

el escaso éxito de los contratos indefinidos está encima de la mesa el empleo parcial pero es que además el empleo parcial asociado con el incremento de

no se pagan estamos sufriendo el encadenamiento de los contratos temporales estamos sufriendo la temporalidad que no solo se ha mantenido

de la reforma laboral estamos sufriendo el empobrecimiento de la población asalariada el incremento de la desigualdad y el mantenimiento de la dualidad ahí están los datos muchos de ellos son válidos tanto para euskadi como para de españa y desde luego nosotros somos de los que pensamos que esta situación no se va a cambiar si no se produce una nueva reforma laboral que eche para atrás la reforma laboral aplicada por el gobierno del pp la reforma reaccionaria y regresiva puesta en marcha por el gobierno del pp y no se solucionará mientras no se lleve a cabo un cambio en el modelo productivo y mientras no se implementen determinadas políticas sociales y económicas que den la vuelta a la situación ya digo

los datos la precariedad el incremento del empleo temporal el encadenamiento de los contratos temporales la bajada del sueldo de los trabajadores

el cincuenta y cinco por ciento de los casi seis millónes de desempleados que existen en españa no tiene siquiera finalizada la educación secundaria o el hecho de la devaluación interna vía rebajas salariales que se está produciendo y a pesar de que determinados márgenes empresariales se están incrementando

al que nos enfrentamos y ante este escenario yo creo que lo que hacen falta son políticas económicas de alcance

que incluya también el contrato único indefinido que creo que en los últimos tiempos cada vez más gente viene a defender y también hace falta

es la convocatoria cuanto antes de la mesa de diálogo si todos somos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos quizás podamos sacar adelante esta situación dar la vuelta a esta situación partidos políticos gobiernos empresarios y sindicatos todos remando a una para cambiar el modelo productivo

eskerrik asko berriz ere legebiltzarburu andrea a favor del diálogo social todos los representantes de los diferentes grupos nos hemos pronunciado a favor del diálogo social y

se va a convocar cuando nosotros hablamos de condicionantes no hablamos de que haya sindicatos que decidan no ir

cuando hablábamos de condicionantes nos referíamos más a como ha explicado la señora zulaika ha leído un email a nosotros

en varias ocasiones se nos había manifestado que dada la situación en la que se encontraba toda la negociación colectiva que no veían

rotas las posibilidades de negociación y de llegar a ningún acuerdo y por eso y solo por eso ha estado el gobierno trabajando hablando en reuniones bilaterales

clima esa confianza que permita que se convoque la mesa e irán los que quieran ir y tenemos claro que no todos van a acudir por lo que están diciendo

la menor duda que a este gobierno no le va a temblar el pulso en convocarla aunque haya sindicatos

ya están diciendo que no van a ir ese será su problema la sociedad les juzgará a ellos por no quererse sentar a hablar de lo que y de la problemática

de los y las trabajadoras y por eso insisto el gobierno ha avanzado mucho en este sentido ha mantenido muchísimas reuniones con la patronal con los sindicatos

y aunque usted no lo crea señor itxaso estamos convencidos que este año será el año del diálogo social y la mesa será convocada más pronto

le resulte todo tarde zulaika andrea nik uste gure postura gure jarrera

en la negociación también la representante del partido popular y el

a la misma por supuesto y por cierto cuando

hablaba de un foro permanente de diálogo y eso el gobierno lo tiene abierto con todos los sindicatos que han querido hablar e insisto que la mesa de diálogo social no se preocupe señor itxaso que va a ser convocada que tarde y además porque todos estamos abogando por ello porque haya un diálogo con todas aquellas partes que quieran participar las que no quieran y se autoexcluyan ese será problema de ellas

gracias señora presidenta muy brevemente porque yo creo que está

la tenacidad sea mala no lo he dicho pero es verdad que usted con esto es muy tenaz señor itxaso

y yo estoy de acuerdo con usted en que para acordar hay que tener voluntad

pero sí que hay que decir que es cierto que en

se están creando más contrataciones temporales un quince por ciento más que hace un año pero también contrataciones fijas señor maneiro también un seis por ciento más

y aquí bildu con relación a este tema nos ha dicho lo que nos

que la mesa no puede reunirse si no se dan las condiciones y garantías suficientes para la participación claro pero quién dice

condiciones yo no solo no voy a ir sino además lo que pido es que la mesa no se celebre

lo que no se pueden hacer es esas posiciones maximalistas de o condiciones o voy yo o no hay mesa es que eso realmente

por el diálogo social eso no es apostar por el diálogo social y yo me alegro que el partido nacionalista vasco que es el partido que apoya al gobierno diga que

se va a convocar porque nosotros lo hemos dicho en otras ocasiones nosotros podemos compartir y se lo hemos dicho en otras ocasiones solo faltaba que la mesa fuera un elemento fundamental para la creación de empleo y no se convocase

que la mesa no puede quedarse reducida a una foto también pero lo que tampoco puede impedir que en esa foto no estén todos que no se convoque la mesa

tienen posturas absolutamente enrocadas y el fracaso no se dará porque haya partes que no vayan el fracaso se dará si las partes no consiguen llegar a un acuerdo pero como he dicho antes

para algunos esta voluntad no existe no existe porque para algunos

detrás de una pancarta y como mejor se defienda a los trabajadores es estar detrás de una pancarta

deben tener en cuenta y deben ver quién defiende mejor sus intereses

quien pelea con la otra parte para que haya un avance en los derechos sociales o quienes no quieren acudir a una reunión y lo único que quieren
es estar detrás de una pancarta creo creo que no tengo que decir qué postura es mejor nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea eztabaida

en ninguna de las enmiendas realizadas que acabe con la destrucción de empleo en el sector público y que por lo tanto genere empleo y empiece a recuperar

hechas las medidas aplicadas hasta ahora y se insta cambiar las políticas pero no se define

y cómo se tienen que realizar el partido popular también

a seguir destruyendo empleo en el sector público como hasta ahora porque

si hacer eso se piensa que es razonable pues se insta a seguir haciendo lo mismo

partido nacionalista vasco tengo que decir que las propuestas que realizan son muy similares pienso que no será ninguna casualidad son muy similares en cuanto al orden del día que proponen para la próxima reunión de mesa general porque es un orden del día puro no hay más no hay propuestas concretas a realizar por cierto orden del día que creo que las mesas de la administración pública

una y tras otra los mismos puntos de debate en todas las reuniones

a la señora arrondo no le gusta nuestra enmienda pero a nosotros sí que nos gusta mucho nuestra enmienda y pensamos que es la mejor y pensamos que

para salir de la situación en la que se encuentra la señora arrondo considera que la creación de empleo público además de la independencia de euskal herria

que nos salvarían del infierno y nosotros pensamos que no que hay que ir más allá que hay que hacer una visión global de las políticas económicas y sociales que se han implementado en los últimos tiempos

los derechos de la mayoría los derechos sociales los derechos de los trabajadores empezar a crear empleo y salir de la situación no creemos por lo tanto que ni la independencia de euskal herria ni la creación de empleo público porque sí aunque no se diga cómo vaya a salvarnos de la situación en la que nos encontramos de ahí nuestra enmienda y por esto y

algún tipo de acuerdo o habrá algún tipo de acuerdo entre los distintos grupos yo me ceñiré a defender nuestra enmienda qué es lo que nosotros décimos pensamos que este parlamento debe las medidas impulsadas por el gobierno vasco y por el gobierno de españa que han incidido o inciden injustamente en los derechos laborales y salariales de las personas trabajadoras

proponemos también que este parlamento muestre como ya lo hizo en su momento por cierto su reconocimiento a la labor desempeñada por las personas que trabajan en administración pública pilar fundamental en la prestación de los servicios públicos que se prestan euskadi y proponemos instar al gobierno vasco a defender una política económica para la creación de empleo estable digno y de calidad y unas políticas públicas que prioricen la modernización de euskadi el fortalecimiento sin recortes del estado del bienestar y la atención a los ciudadanos que se encuentran en situación

o sensible quizás a alguno le pueda parecer una enmienda excesivamente genérica pero en fin teníamos la opción de presentar esta enmienda o

el propio programa completo de upyd hemos pensado que lo más razonable era presentar esta enmienda en fin creo que se trata que no estamos de acuerdo con los recortes sociales llevados a cabo por los distintos gobiernos recortes sociales llevados a cabo por el gobierno de españa que seguimos padeciendo recortes impulsados también por parte del gobierno vasco y en concreto aquellos que han afectado al conjunto de la sociedad y especialmente a los sectores más vulnerables y hablamos de los recortes habidos en educación recortes impulsados por el gobierno de españa pero también

en el uso de sus competencias autonómicas y hablamos también de los recortes habidos en sanidad impulsados por el gobierno de españa que seguimos padeciendo pero también recortes impulsados por el gobierno vasco en el uso de sus competencias y los recortes en la ley de dependencia impulsados por el gobierno de españa y la reforma laboral reaccionaria e injusta o los copagos sanitarios o la reforma de las pensiones o las limitaciones en el acceso

por este gobierno en el uso de sus competencias todo esto nos oponemos nosotros y nos oponemos también a aquellos recortes que han afectado a los trabajadores de la administración porque son injustos porque son inútiles

en la que nos encontramos podemos hablar de la reducción de sueldos podemos hablar de la congelación de sueldos podemos hablar de la ampliación de jornadas podemos hablar de bajas que no se cubren de vacaciones que no se cubren

en la administración recortes impulsados por el gobierno de españa y recortes también impulsados por el gobierno vasco las condiciones de los empleados públicos implica empeorar los servicios públicos menos personal supone menos servicios

peores servicios públicos y nosotros queremos defender y ahí están todas nuestras iniciativas tanto los derechos salariales derechos laborales

los derechos laborales derechos salariales de los empleados públicos para qué para garantizar sus derechos y también para garantizar

como en el conjunto de españa eh bildu decía que no hay propuestas concretas para crear empleo público nosotros venimos planteando una serie de propuestas profundas radicales en el sentido de que van

y euskadi ya digo no están reflejadas en esta enmienda pero las hemos defendido en innumerables ocasiones tanto aquí

algunas de estas medidas corresponderían al gobierno de españa y otras muchas medidas corresponderían al gobierno vasco

una reforma del estado autonómico podía llevar a cabo una nueva reforma laboral que acabara con la reaccionaria reforma laboral actual y en vigor

e innumerables otras medidas que nosotros hemos puesto encima de la mesa en los últimos tiempos y el gobierno vasco debería tomar medidas para reformar el entramado institucional para reducir las duplicidades para reducir las ineficiencias podía llevar a cabo propaganda medidas concretas para llevar a cabo la racionalización del sector público societario para cambiar la fiscalidad para cambiar o mejorar

abogar por las inversiones productivas acabar con las políticas de recortes contra los ciudadanos son un cúmulo de medidas que deberían ponerse en marcha no basta con decir que hay que crear empleo público ni hay que defender la independencia de euskal herria porque esto es lo que nos llevará a una situación mejor no son

se niegan a hacer y pensamos que todo esto es lo que habría que hacer hay que tener una visión global de cómo está el país para cambiar

debería cambiarse estas son por lo tanto nuestras propuestas que no caben evidentemente en una enmienda de totalidad

como el que se plantea hay que defender los derechos de los empleados públicos nos hemos posicionado a favor de ello en innumerables ocasiones y pensamos que para defender

todo esto que he señalado es lo que se debería hacer es decir habría que dedicar los recursos públicos

no ha mantener instituciones u organismos inútiles si no a fortalecer el estado del bienestar el gasto social los derechos de los ciudadanos los derechos de los empleados públicos etcétera etcétera o no privatizar servicios públicos esenciales todo esto es lo que debería hacerse de ahí nuestra enmienda todo esto es por lo tanto

y para garantizar las condiciones laborales de los trabajadores en general y las de los empleados públicos en particular de ahí nuestra

señor consejero el debate al final es el mismo al gobierno de españa al final estamos hablando del gobierno vasco pero bueno siempre el objetivo es

dice la señora arrondo que no es optimista la verdad esque no puede serlo porque viendo las cosas como las plantea

el optimismo en ese tipo de planteamientos nosotros entendemos que la moción

está muy mal enfocada está mal encuadrada

yo no creo yo no soy del gobierno vasco ni apoyo al gobierno vasco ni ahora ni antes

que exista una política de destrucción de empleo orquestada desde nuestra administración autónoma

el de todos los días ya estamos acostumbrados mire será una política

y aunque el gobierno hace muchas cosas mal desde luego no creo que caiga en ese error

ni el anterior y como no lo creo yo no puedo considerar que su iniciativa

ya le he dicho antes esté bien encuadrada ya desde el inicio bien enfocada para conseguir acuerdo señora arrondo está fatal planteada

está bien claro que la iniciativa es absolutamente improcedente es estéril

yo supongo que a los sindicatos no les habrá gustado nada esta moción que usted plantea además yo creo que suplanta usted su papel

usted no quiere impulsar la negociación colectiva usted

quiere dirigir quiere controlar desde la imposición la negociación colectiva

dirigismo e intervencionismo tradicional en bildu hacer de este parlamento una cámara no de control de la negociación e impulso al incumplimiento de la ley

se ve en esta moción que usted presenta incluso incumplimiento contractual que es lo que usted pide es decir incumplimiento legal incumplimiento

están sobre la mesa de negociación ahí es donde hay que debatirlas y hay que negociarlas además algunas de las cuestiones que usted plantea horas por ejemplo ya están sobre la mesa se debata de estos temas aquí se ha hablado mucho dejen ustedes trabajar a empleadores y trabajadores

desde los análisis de la situación buscando fórmulas y puntos de acuerdo y vuelvo a decir no sea usted dirigista intervencionista y

bildu aquí no es un agente dejen ustedes trabajar a los agentes dejen ustedes trabajar a los representantes de los trabajadores y de la administración

eso es lo que tiene que hacer para conseguir acuerdos señora arrondo

lo que usted dice y como ya me imagino por lo que pone la iniciativa no va a ser apoyada por el pnv y psoe

en la línea de flotación así que en ese sentido es absolutamente estéril lo que usted plantea en esta cámara nosotros hemos querido presentar una enmienda de totalidad nuestra enmienda de totalidad está

de cara a que en la negociación no haya imposición no haya dirigismo garantías está bien claro que efectivamente usted ha recordado que nosotros instamos al gobierno vasco a que

que pedir al gobierno vasco respetando la seguridad jurídica de los acuerdos respetando

el gobierno y las mesas de negociación que garanticen esa seguridad jurídica de los acuerdos que se alcancen en lo relativo a todas las cuestiones de las que se pueden hablar horas calendarios ofertas públicas de empleo sustituciones medidas para favorecer la conciliación familiar y todos esos aspectos

de la negociación laboral normal yo creo que además hay una cuestión que ustedes no entienden ustedes no acaban de entender no quieren entender porque quieren lo contrario quieren el intervencionismo el dirigismo la supervisión permanente el control público permanente al final eso lleva lamentablemente a falta

manejan con facilidad ahora lo fundamental no es la cuestión

de esta administración ni ninguna otra lo fundamental es que los poderes públicos generen las condiciones óptimas para generar empleo público o no señora arrondo
se ha equivocado usted con la moción muchas gracias eskerrik asko barrio jauna